en este parlamento la toma en consideración de tres proposiciones de ley idénticas y agrupadas iniciativas

legislativas ante las cortes generales del estado y relativas a la alteración de los límites provinciales para la segregación de los ayuntamientos

de la provincia de burgos y su incorporación al territorio histórico

se trata desde el punto de vista de nuestro grupo primero de dar cauce a una vía hasta ahora no explorada que puede servir

y en nuestra opinión para corregir también un despropósito social cultural administrativo y económico que dura ya demasiado

de que este parlamento haga suyo el sentir mayoritario de los habitantes de treviño expresado en esta ocasión en los acuerdos plenarios

de fecha ocho de marzo en los que se afirma tajantemente que quieren integrarse en el territorio histórico de álava optando por ello

sin ningún voto en contra la propuesta que estamos tratando tiene su fundamento jurídico en el artículo ciento cuarenta y uno punto uno de la constitución

que cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las cortes generales mediante ley orgánica hasta ahora

se han soportado en lo preceptuado en el artículo ocho del estatuto de autonomía del país vasco pero estos intentos han topado siempre con lo instituido asimismo en la disposición transitoria tercera del estatuto

esta disposición impide de facto a los treviñeses y treviñesas cualquier posibilidad

que hoy presentamos puede ser la solución jurídica y si hay voluntad también la solución política para que la población treviñesa

el cauce adecuado para satisfacer sus ansias mayoritarias de integración en el territorio histórico alavés las autoridades

de treviño y de la puebla para no ver obstaculizado el procedimiento de integración han adoptado una iniciativa inteligente y plenamente conforme a derecho dirigirse a este parlamento

su punto de vista favorable a la integración del condado en álava sino además para que esa proposición se traslade obviamente a las cortes generales

ha manifestado su voluntad de segregación desde mediados del siglo diecinueve seis veces en los últimos cien años

tres en los últimos treinta hablamos de un enclave como todos ustedes saben que está a diez kilómetros de vitoria gasteiz y a cien kilómetros de burgos un enclave

quieren y además tienden a obtener en la práctica sus servicios educativos de salud comerciales de ocio culturales en álava

etcétera a vitoria gasteiz y por muchos informes que se emitan tanto desde la diputación provincial de burgos

alegando esas mayores vinculaciones históricas sociales culturales y económicas

la terca realidad es la que es y es precisamente la contraria los acuerdos municipales de treviño y de la puebla

responden a causas objetivas y subjetivas entre las objetivas

como ayuntamientos de prestar unos servicios públicos que satisfagan adecuadamente las demandas de su población haciendo bueno además el principio de continuidad territorial en el establecimiento de las administraciones públicas

recoger la voluntad de sus ciudadanos y ciudadanas

y de la que estos ayuntamientos con sus acuerdos no hacen

estos acuerdos son como digo expresión del sentir

y que afecta además a todas las diferentes maneras de pensar este tema no debe ser reivindicación particular

este tema no debe ser tampoco un choque de trenes entre dos comunidades autónomas diferentes este tema debe ser y lo es un problema

y nosotras a todos señores del partido popular lo que nos toca es dar cauce y respuesta

por eso creo sinceramente que el protagonismo en este debate no le corresponde hoy a ningún grupo político de los que conformamos esta cámara

hoy debe ser de los treviñeses y treviñesas y de su propuesta de solución este parlamento señorías tiene la oportunidad de dar un paso importante en la resolución de este conflicto territorial es nuestra competencia y es nuestra responsabilidad

un pronunciamiento unitario de esta cámara por ello

a todos y a todas el voto favorable a esta toma en consideración eskerrik asko eskerrik asko

como un problema colectivo el cual nos atañe a todos y a todas y en particular a los habitantes de araba

trebiñu es la octava cuadrilla de araba de hecho pero sin derecho puede que madrid vuelva a oponerse queriendo sostener un anacronismo que no hay por dónde cogerlo hasta ahora ya hemos visto dónde han acabado todas las vías que han pasado por castilla león y madrid pero nosotros y nosotras no nos vamos a quedar de brazos cruzados no podemos

mayoritaria de las personas de treviño cualquier decisión que no sea la que ellos y ellas hayan decidido nuestro compromiso

derechos que nos corresponden al resto de vascos y vascas tanto a nivel social cultural

arabarrak eta euskal herritarrak direla como he comentado antes eh bildu va a respaldar y a impulsar la última iniciativa puesta en marcha

con el deseo de que una vez por todas se respete la voluntad de las personas que viven

señora presidenta señorías una vez más estamos aquí en este parlamento abordando el asunto de treviño y yo creo que lo razonable sería empezar por resaltar qué hay de nuevo qué es lo nuevo que nos trae a este debate parlamentario hace algunas semanas algunos meses los representantes institucionales del condado de treviño de sus ayuntamientos

una vía no explorada hasta la fecha para tratar de resolver lo que políticamente es una voluntad y una decisión

unitaria de todas las fuerzas políticas que estamos en este parlamento hemos venido reiterando desde hace mucho tiempo y es coincidir con la voluntad de los trebiñeses y de las trebiñesas en que ese enclave pase a formar parte

del territorio histórico de álava y de la comunidad autónoma del país vasco muchos han sido los intentos que se han hecho distintos los procedimientos y siempre se ha terminado en el empate o en el bloqueo úsese la expresión que

adecuado bien en estos momentos se plantea a iniciativa como he dicho de los representantes institucionales de los ayuntamientos de treviño que este parlamento tome la iniciativa

a las cortes generales una ley orgánica para que se pueda resolver teniendo en cuenta los intereses y los criterios de todo el mundo pero para que desde ese espacio se pueda resolver este asunto en el sentido favorable todas las fuerzas políticas alavesas y vascas hemos manifestado y también como he dicho los representantes institucionales es evidente que existe en nuestro sistema de derecho una posibilidad de actuar es cierto que hay distintos procedimientos y distintos caminos algunos han dicho públicamente que este camino es un camino peligroso

porque cualquier procedimiento que se quiera utilizar desde el punto de vista del derecho democrático si está contemplado en sus leyes no tiene de peligroso absolutamente nada

si no me equivoco del diputado general de álava de hace unas escasas horas utilizar la legalidad para poder abordar

que tiene unas raíces políticas sociales culturales etcétera es lo más legítimo y lo menos peligroso que puede existir en un sistema democrático y en función de su saber y entender estos representantes institucionales de los ayuntamientos condado de treviño nos han pedido que les ayudemos a iniciar esta fórmula legislativa a través de ley orgánica por cortes generales esto es lo que estamos haciendo hoy aquí y esto lo estamos haciendo

importante resaltar la primera que lo hacemos en un tiempo en un momento en un espacio en unas fechas en las que la convivencia la situación política del país vasco de álava ha cambiado extraordinariamente es cierto que si alguno

pero es evidente que hay

otra posibilidad de hacer debates otra forma de encontrarnos

este es un elemento que también ayuda y contribuye a que con menos tensiones con menos exageraciones y con menos utilizaciones a veces

organizativo por otras cuestiones ajenas en este momento se pueda abordar en su esencia se pueda abordar si realmente

tiene alguna razón de ser que pueda pertenecer a álava que pueda pertenecer al país vasco y que lo pueda hacer de acuerdo a un procedimiento legal y

ningún agravio y ningún problema entre diferentes comunidades

las cortes generales tienen la facultad de hacerlo es más me sorprende el temor de un partido que tiene mayoría absoluta

las políticas que practica pero bueno que ellos asimismo tengan temor a una cámara en la que tienen mayoría absoluta para poder conducir correctamente

esta propuesta que nos hacen los ayuntamientos me parece realmente

hemos querido que esta iniciativa fuera unitaria que fuera

para eso habíamos manifestado en reiteradas ocasiones no sé si con la boca pequeña o con la boca grande que estábamos de acuerdo con la intervención

convocamos reuniones con los representantes institucionales convocamos reuniones entre los partidos los convocó un partido el otro y el otro por si alguien tenía estos problemas de relación en función de las siglas

portavoces de otros grupos a través del teléfono para que por lo menos nos dijeran

señor maneiro hace así un gesto de extrañeza usted fue unos de los perseguidos en concreto

no tengo que responsabilizar a nadie más y así como me suele resultar fácil contactar con usted en ese caso me resultó imposible y la reunión estaba convocada

y retrasamos la reunión durante bastantes minutos hicimos también los recados en su grupo para que

pudiera darse por enterado de alguna de las maneras lo mismo hicimos con el señor barrio bueno

unitariamente aquí porque como se ha expresado nadie quería trabajar en una idea de protagonismo de hecho por eso se han presentado también las tres propuestas para que tuvieran a pesar de todo el mejor encaje el mayor encaje

en fin estas cosas que en esta cámara suceden y que son muy importantes y de mucho nivel que nos dan una enorme madurez a todos nosotros porque en vez de fijarnos en el contenido de la propuesta política nos fijamos en el portador de la propuesta política es decir jugamos aquí un poco a la casa de las fiestas

cuál sea el disfraz cuando la esencia de este parlamento debiera de ser

intentamos como decía que fuera unitaria no ha sido posible pero no desperdiciamos esta oportunidad ustedes tienen la posibilidad de hacerlo hoy también aquí

porque el partido popular no sabía si sí o no o todo lo contrario y upyd espera la explicación de voto que sabe que no tiene posibilidad de replica

cuando un debate tiene un cierto calado para poder hacer un debate de ideas donde corresponde que es en esta tribuna en cualquier caso el procedimiento está en curso

hoy con unanimidad o sin ella va a tomar la decisión de que se inicie ese trámite legislativo en cortes generales para que haya la posibilidad

este asunto y los socialistas estamos muy satisfechos

este asunto aquí de esta manera de haber podido ser útiles a los ayuntamientos del condado de treviño en su propuesta en su aspiración y espero que si el debate ha de servir para cambiar las ideas

y que quienes están con un voto raro pongan un voto favorable a esta propuesta muchas gracias eskerrik asko prieto

gracias señora presidenta señorías buenos días de nuevo

en este turno que va a ser de abstención por las razones que explicaré también quiero antes de nada saludar a los representantes institucionales alcaldes personas que han venido

y quiero decirles que reconozco ante todo su esfuerzo y su determinación y que agradezco muchas cosas

su constancia su prudencia y su confianza en la política y en las instituciones democráticas eso lo han demostrado en su trabajo durante todos estos meses

que esperamos lleve más pronto que tarde a una solución definitiva ya que con la racionalidad y con el sentido común que la cuestión merece treviño

y esta anacrónica y desproporcionada realidad deje paso a otra más coherente y lógica

ellos no hay posiciones partidistas y lo sabemos

son para realizar ese cambio administrativo que los dos ayuntamientos por amplias mayorías han solicitado y en eso tienen razón y compartimos esa idea está bien claro que esta iniciativa planteada por tres grupos parlamentarios se va a aprobar

en la toma en consideración queremos que treviño

treviño es álava esencialmente y esa es la posición que asumimos y que queremos que se materialice lo antes posible pero tenemos en cuenta a la opción parlamentaria planteada y

parlamentaria planteada y una consideración difícil de superar en el terreno

en relación con la iniciativa que se plantea el hecho de que con una iniciativa de un parlamento autonómico se pretenda modificar la realidad estatutaria de una comunidad autónoma vecina supondría para nosotros un precedente cuando menos cuestionable sí que es cierto que la potestad

pero el camino emprendido con esta iniciativa puede tener un reflejo en otras iniciativas parlamentarias de comunidades autónomas vecinas que quieren alterar aspectos controvertidos para ella

sé que a los partidos políticos que impulsan aspectos como el desarme foral y la progresiva desarticulación de hechos como el concierto económico nuestras instituciones competentes y competencias fruto de los derechos históricos eso no les importa

pero a nosotros sí no veríamos lógico que un parlamento de una comunidad autónoma vecina pidiese en una

la supresión de instituciones forales ancladas en nuestro estatuto de autonomía por ejemplo no lo veríamos lógico sabemos que lo que nos ocupa y esas posibles tentaciones de otras comunidades poco o nada

que se utiliza en este momento sí que puede volver a utilizarse aunque sea para algo distinto en el sentido que yo he descrito señorías entendemos que la existencia

como treviño no es racional administrativamente ni eficiente ni es bueno para las relaciones entre instituciones y ciudadanos

en desacuerdo con las instituciones de castilla y león por el tema de treviño no entendemos la actitud cerrada de esa comunidad autónoma además saben que treviño será álava antes o después pero sí creemos que una solución

de otra manera podría ser la general la de hacer desde las cortes generales un planteamiento de solución general para el conjunto de los enclaves en españa una solución para racionalización y la mejora de administración local

históricos y territoriales como este que nos ocupa como es el de treviño nosotros pedimos instamos exigimos un acuerdo en el congreso de los diputados o en el senado sobre

sería para nosotros el marco adecuado para superar este contencioso y la vía para mejorar administrativamente la vida de los treviñeses nosotros seguiremos trabajando desde el partido popular vasco en estas claves como recientemente ha puesto de manifiesto el diputado general de álava en el último pleno de política general cuando dijo desde la máxima representación institucional alavesa que respecto a treviño tengo que decir que

no por razones políticas y menos aún por nacionalismos que no aportan nada creo que la existencia de treviño como enclave va

y que nos exigimos todos bien para nosotros una declaración inequívoca en ese sentido nos hemos tratado de pronunciar en este pleno y que desde luego para mi grupo

otros ejemplos o históricos la ponencia que trabajó en el senado y que culminó sus trabajos en un informe aprobado

en sus conclusiones de vías a tomar para desbloquear el asunto de los enclaves efectivamente fue una ponencia con un trabajo insuficiente pero sí que se hablaron en sus conclusiones de vías y entre ellas estaban las legales bien

los trabajos de esa ponencia en la cámara territorial del estado en la cámara alta con el fin de aprobar una ley de enclaves o un planteamiento de desbloqueo de las situaciones

también podríamos incluirlo y efectivamente entendemos nosotros que debe de ser así en los debates de la ley de racionalización y mejora de la administración local

desde el grupo popular vasco trabajaremos para que treviño sea álava muchas gracias eskerrik asko

bien tenemos solamente posibilidad de pronunciarnos en esta réplica respecto del posicionamiento

se reserva su intervención para la explicación de voto mire señor barrio se lo digo con todo cariño

a escurrir el bulto yo soy de los que cree que cada vez más en política desgraciadamente lo que tenemos que hacer es gestionar contradicciones

les resulta absolutamente imposibles de gestionar les pasa con treviño les pasa con garoña les pasa con el aeropuerto de foronda les pasa con el concierto económico que usted aquí parece

y es que señor barrio defender una cosa y la contraria además de resultar imposible es que no resulta creíble y eso es lo que les ocurre

ante situaciones de este tenor en las que se ven afrontados a una serie de contradicciones lo que suelen hacer es generar una especie de ceremonia de la confusión de ceremonia de la contradicción y así podemos ver aspectos tan curiosos en las posiciones del partido popular respecto al tema de treviño como lo que dicen por ejemplo su representante

dice en treviño lo que ha pasado en los últimos treinta y tantos años es que ha habido una especie de colonización vasca eso dice un representante del partido popular en burgos el presidente del gobierno español el señor rajoy

el interés general de los ciudadanos y encontrar soluciones a los problemas pues aquí tiene una gran oportunidad en cuanto esto llegue a las cortes un concejal suyo en el ayuntamiento de la puebla de arganzón

este asunto no es viable en cuanto burgos recurra quedará en nada

eso dice un concejal del partido popular en la puebla

de uno de los ayuntamientos del condado y concejal en estos momentos dice tengo que votar abstención pero el cuerpo me pediría votar a favor de la vía que plantean por mayoría ambos ayuntamientos el señor alfonso alonso portavoz en el congreso de los diputados

y ya el diputado general de álava el señor javier de andrés

esta vía no esta vía yo no la veo

porque es una vía peligrosa dice textualmente es una vía peligrosa

la reforma de la administración local para solventar el problema de los enclaves y dos el que unilateralmente como explicaba usted aquí usted hace suyos los argumentos que ha dicho el señor diputado general de álava

de la reivindicación de la integración de treviño en nuestro territorio dice eso mire señor barrio yo le tengo que decir reforma de la administración local y por qué si lo tienen tan claro no han planteado ustedes desde el primer borrador en madrid la posibilidad de que en esa ley de sostenibilidad y racionalización de la administración local

no es cierto no lo han hecho usted viene hoy aquí a justificarse

y el peligro que tiene que desde una comunidad se pueda variar el estatuto de autonomía de otra pero hombre por favor pero qué están haciendo ustedes diariamente en madrid con su mayoría absoluta

claramente establecidas en el estatuto de autonomía del país vasco señor barrio o sea que les preocupa que se pueda alterar el de castilla y león pero no les preocupa a ustedes con su mayoría absoluta

unilateralmente de la comunidad autónoma del país vasco mire la cruda realidad señor barrio es que el partido popular a nivel estatal

castilla y león que lo que le puede interesar el país vasco y en concreto álava y a ustedes

y venir aquí y yo reconozco que usted hoy aquí tiene que hacer un verdadero papelón pero le voy a decir una cosa muchas veces y con esto termino señora presidenta

cuando se le confronta con alguna de esas contradicciones suele decir yo es que soy parlamentario vasco lo que hagan en otros sitios

que hoy ejerzan de eso que ejerzan de parlamentarios vascos

alavés que no siga la estela o que no doble la cabeza ante las pretensiones de castilla y león y por lo menos

de la toma en consideración luego en comisión hagan lo que quieran pero por lomenos a favor de la toma en consideración de esta proposición que como decía en mi primera intervención

ya se ha dicho hoy y me consta que los ayuntamientos de treviño

un acuerdo unánime favorable a la propuesta que nos hicieron a todos los grupos parlamentarios esta

de ningún grupo en concreto sino es la tramitación de una propuesta realizada por los ayuntamientos de treviño pero parece ser que no

de cariño que xabier agirre pero decirle behin baino

presidenta señor barrio la verdad que esta es una de sus características

ha empezado saludando a los representantes institucionales de treviño pero yo le sugiero que

y a lo que realmente han venido no es a recibir cortesía sino a recibir un apoyo político y poder

que es perfectamente legal que es el inicio de una tramitación para hacer una ley orgánica en las cortes generales donde de nuevo usted como ha manifestado hoy aquí tiene miedo a su partido a su gobierno a la mayoría de esas cortes generales porque siendo ellos los que van a tener

de hacerla de tramitarla resulta que le parece a usted también un instrumento peligroso que puede acabar utilizándose de mala manera para otros usos y costumbres

me gustaría saber cuál para saber si los temores son fundados o infundados pero en base a esa alambicada explicación al final usted lo que hace

a los ciudadanos de treviño es adiós y yo creo que esto es lo que por lo menos en este turno de réplica le solicitaría

lo reconvirtiera que reaccionara y que lo resolviera de otra manera mire usted lo que nos ha planteado aquí es algo que ya está

y es que cuando usted tiene un problema si no tiene la solución para ese problema puede crear otro y usted nos dice bueno lo de treviño llevémoslo a cincuenta enclaves que si lo de uno ya tiene su complicación

pues lo de cincuenta seguramente será mucho más fácil es decir el encaje bueno

por cierto procedimiento que ha sido utilizado el de los enclaves ya en el senado en otras ocasiones y que no ha dado ningún resultado mire señor barrio usted me recuerda a las navidades

a eso que suele hacer entre otros el señor damborenea

si no nos vemos que pasen ustedes buena noche lo hicieron el otro día convocaron desde el ayuntamiento la manifestación de garoña

y eso que eran ustedes los convocantes y a los treviñeses y treviñesas les vuelven a decir hoy lo mismo si no nos vemos

porque la política no pasa por ustedes eskerrik asko prieto jauna

gracias señora presidenta y brevemente yo creo que nosotros ya hemos manifestado en la intervención que hemos hecho
nuestra posición nuestra posición clara definitiva nuestras reservas en relación con la iniciativa

a repetir usted la verdad es que es experto muchas veces en frivolizar los debates yo creo que hay que apreciar o también alguien puede apreciar la evolución de las posiciones el avance que se dan en relación con las posiciones que tratarán de influir

en el que treviño sea álava lo he dicho antes a nosotros no nos gusta la actitud cerrada de castilla león discrepamos de la misma y además es que ellos saben lo décimos que tarde o temprano treviño será álava bueno nosotros

evolucionamos también hacemos discursos y también nos comprometemos en relación con esas cuestiones lógicamente también tenemos nuestras dudas y también valoramos las iniciativas que se nos plantean yo no tengo ningún miedo señor prieto a mi partido o a mi gobierno las cosas las

y en ese sentido estamos convencidos de lo mismo pero en esta cuestión

de otras posiciones territoriales de mi propio partido hoy mismo lo he dejado claro en mi intervención déjenos por favor seguir

nuestro planteamiento de la misma manera que el señor agirre que me diga el señor agirre

últimamente a ver quién escurre el bulto yo

no puede hacer este discurso hoy de la misma manera que lo hizo hace diez años o hace quince años yo creo que usted que ha sido diputado general de álava debiera de apreciar cómo se anda en ese sentido y si usted lo que quiere de verdad es que treviño

de apreciar esos movimientos esos pasos esa evolución efectivamente usted lo debiera hacer y no descalificar pues lo que usted ha hecho es simplemente descalificar

yo también podría decir que ustedes no han hecho nada cuando usted era diputado general no se lo voy a decir

que usted no ha hecho nada cuando era diputado general porque usted podía haber ido

de gobierno y de apoyo presupuestario permanentemente podían haber incidido en la cuestión de treviño lo podían haber hecho usted sí como diputado general podía haber ido donde el señor rodríguez zapatero

podía haberlo hecho podía haber incidido ya se preocuparon sobre otras cuestiones sobre algún club de fútbol y alguna cosa así no

bueno ahí está el señor rojo señor prieto fue presidente del senado ocho años qué hizo en relación con treviño y es un alavés que usted ha repartido no hizo

nada y presidía la cámara territorial del estado la cámara territorial donde un aspecto una cuestión sobre esta podía haber tenido incidencia

no frivolice señor rojo no frivolice señor agirre que usted

vuelvo a decir nosotros mi grupo quiere que treviño

cuanto antes el planteamiento sobre el instrumento jurídico está ahí déjennos discrepar en relación con este tema yo ya le he manifestado mis dudas en relación con que una comunidad autónoma de esta manera influya

en la modificación de facto de un estatuto de autonomía de otra no nos ha parecido que el tema

favoreceremos desde el partido popular del país vasco cualquier iniciativa en el sentido de seguir trabajando

sí gracias presidenta vamos a ver no he intervenido en el turno

porque no vamos a votar a favor de esta iniciativa y tampoco en el turno en contra porque estamos a favor de la incorporación de treviño en álava y por lo tanto uso la palabra

el voto que tenía que haberse dado ya y efectivamente ese voto va a ser la abstención por las razones que voy a intentar de explicar y de exponer

comparecimos en rueda de prensa en este parlamento el coordinador del consejo territorial de upyd de castilla y león y el portavoz de upyd en euskadi y miembro del consejo de dirección nacional de upyd es decir un servidor para explicar la postura de upyd en relación a treviño en esa rueda de prensa dijimos lo siguiente dada la experiencia acumulada en los últimos años en relación a la prestación de servicios que reciben los habitantes de treviño y la situación del enclave así como el deseo de sus habitantes expresado en los últimos tiempos de manera muy clara

lógico y sensato es que treviño pase a formar parte de álava y de euskadi es lo que más interesa a los ciudadanos de treviño es lo que dice el sentido común es lo más razonable si defendemos la eficacia y la eficiencia en la prestación de servicios públicos esto es lo que dijimos

un servidor acompañado del coordinador de upyd en castilla y león y dijimos que esta postura la mantiene y defiende upyd en álava

en euskadi y en castilla y león y upyd nacional también considera que lo más razonable y sensato es que treviño pase a formar parte de álava decíamos en esa rueda de prensa que recientemente hemos mantenido y defendido esta misma postura en la diputación de burgos ustedes no pueden decir lo mismo

esta posición en la diputación de burgos soportando incluso insultos del resto de partidos políticos por defender en burgos y eso es lo complicado señor prieto por defender en burgos la incorporación de treviño a álava lo más razonable es que treviño se incorpore a álava por pragmatismo por eficiencia en la prestación de servicios

el partido popular defiende una cosa en álava y otra cosa en burgos una cosa en castilla y león y otra cosa en euskadi por razones demoscópicas

una cosa en castilla y león y otra cosa en el país vasco por razones demoscópicas por razones electorales upyd defiende la misma postura

en el congreso de los diputados y decíamos en aquella rueda de prensa del veinticuatro de junio defendemos por tanto por ser lo más razonable lógico y sensato

a álava para lo que deberán respetarse estrictamente los procedimientos legales establecidos para ello y esta es la cuestión respetando estrictamente los procedimientos legales establecidos para ello hau da

para lo que deberán respetarse estrictamente los procedimientos legales establecidos y ustedes saben mejor que yo lo que dice el estatuto de castilla y león

disposición transitoria tercera con la que nosotros no estamos en absoluto de acuerdo y que si por nosotros fuera

mañana mismo pero esto es lo que dice el estatuto de castilla y león y no podemos olvidar lo que dice y por lo tanto

políticamente estamos de acuerdo y legalmente ustedes quizás lo

es dificultoso problemático el camino elegido nosotros no compartimos lo que dice esta disposición transitoria tercera

pero lo que tienen que hacer ustedes porque tienen mayoría es cambiar ese estatuto de castilla y león modifiquen el estatuto de castilla y león defiendan lo mismo allí que aquí aquí defendemos de manera unánime que treviño se incorpore a álava defiendan esto mismo en burgos y en castilla y león señores del partido popular y señores del partido socialista nosotros dimos allí en la diputación de burgos y nos quedamos solos evidentemente no escurrimos el bulto señor agirre hicimos algo

de treviño en álava nada menos que en la diputación de burgos

en la diputación de burgos a nosotros se nos insultó por ello pero nos parece lo más razonable defender la integración de treviño en álava porque nos parece lo más sensato y lo más razonable pero respetando

y a día de hoy el estatuto de castilla y león que nosotros no lo hemos apoyado ni lo hemos votado dice lo que dice
en todo caso nosotros también esperamos que treviño pueda formar parte de álava cuanto antes será
para los ciudadanos de treviño y es lo que dice sin ningún tipo de dudas el sentido común gracias eskerrik asko maneiro jauna gai zerrendako laugarren puntua mozioa

el pasado veintiuno de junio nosotros hicimos una interpelación al señor consejero señor gatzagaetxebarria sobre dos

uno sobre la legalidad y adaptación de las leyes presupuestarias de la comunidad autónoma a los principios de estabilidad presupuestaria

la ejecución del presupuesto y cómo ese presupuesto y esa ejecución no se estaba adaptando

presupuestaria señor consejero nos dijo que en la presentación del presupuesto fallido para este año era un ejercicio de transparencia y es verdad lo era pero también nos dijo que las obligaciones reconocidas a final de año vamos a intentar que no superen el déficit que se acuerde para dos mil trece es decir

si efectivamente durante la ejecución presupuestaria de este año se están cumpliendo o no los principios y los criterios de ingresos de gastos y de estabilidad que en fin que preceptivamente aunque no estemos adaptados legalmente como reconoció el señor consejero pero que ya nos prometió esa modificación de la leyes tendríamos que hacer posteriormente nosotros planteamos esta interpelación el día veintiuno

esta moción que era muy simple instar al gobierno vasco adecuar el presupuesto prorrogado de dos mil doce a la realidad de los ingresos previstos

especificando qué modificaciones hay para cumplir los principios de estabilidad presupuestaria posteriormente en el mes de julio el día cuatro recibimos una respuesta por escrito del señor consejero digo que la moción la presentamos

y tiempo ha tenido el gobierno si tuviera intención de esa transparencia que practicó

proyecto de presupuestos que luego retiró si esa

que está vigente en estos momentos y la respuesta que recibimos por escrito del gobierno fue

el gobierno vasco no ha dictado ninguna directriz de carácter general en relación a la prórroga presupuestaria del año dos mil trece esto nos lo responden en el mes julio cuya gestión se ajustará al régimen presupuestario de euskadi

de conformidad con las disposiciones vigentes en la materia así como con las contenidas en la ley de presupuestos generales prorrogada

qué nos está diciendo es que el gobierno vasco no ha hecho nada no ha adaptado

el presupuesto prorrogado a la realidad de ingresos y gastos y con qué nos encontramos

en nuestro ejercicio de transparencia consiste en que el parlamento tiene la ejecución a treinta y uno de mes de los meses se va ejecutando yo la

es la del treinta y uno de julio en esa del treinta y uno de julio en esa ejecución

sigue siendo exactamente el mismo que el digo como cantidad global

el presupuesto actualizado a treinta y uno de julio cuando el propio el señor consejero ya nos reconocía la interpelación y en el propio proyecto de presupuestos

aumentando las posibilidades de déficit y aumentando tal nos iban a faltar un mínimo

seiscientos setecientos u ochocientos millónes para cumplir este presupuesto que no se iba a poder cumplir entonces nos encontramos y lo voy a poner solo a modo de ejemplo

del programa de inclusión social y lo digo que lo voy a poner a modo de ejemplo

presupuesto inicial y además de cuotas a la seguridad social

presupuesto final seiscientos mil euros presupuesto actualizado

disposición de gasto un millón ochocientos noventa y siete mil euros obligaciones reconocidas novecientos mil euros pagos novecientos mil euros

digamos el ejercicio de transparencia que este parlamento y esta cámara estamos sufriendo yo no voy a decir si es más o menos legal pagar a la seguridad social aunque no haya consignación presupuestaria y ni siquiera se haya molestado nadie en hacer esas modificaciones presupuestarias

ha salido de alguna otra partida y desde luego no ha salido de mayores ingresos sobre los previstos porque todos sabemos

unos ochocientos millónes de euros en el mejor de los casos setecientos millónes de euros

de que exista transparencia ninguna en la ejecución de este presupuesto de hecho nadie en esta cámara es capaz de decirnos esos

cuántos son cuando a día de hoy ya sabemos

con la ampliación de créditos que se pueden establecer y por lo tanto

pasados tres meses de la interpelación que hicimos al gobierno en esta materia ya sabemos que estamos en el mes de octubre

cómo cumplimos todos los principios de estabilidad y los criterios

hemos firmado una transacción con el grupo nacionalistas vascos y con el grupo socialista

que el gobierno adecue la ejecución del presupuesto a los ingresos previstos a su capacidad de endeudamiento y a los principios de estabilidad presupuestaria y a lo mejor si al grupo nacionalista incluido el lehendakari le parece bien

en la ejecución de verdad del presupuesto y podamos comprobar exactamente en qué nos estamos gastando el dinero muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna

presidenta señorías señor damborenea cuando yo leí su iniciativa

me pareció un poco trabalenguas lo que había expresado en la misma tanto en la escueta

en la disposición y después de escucharle aquí yo creo que

sino que el gobierno traiga a esta cámara a través de un proyecto de ley cómo es la ejecución presupuestaria

que haga transparencia sobre las partidas de la ejecución presupuestaria o de la previsión presupuestaria es decir lo lógico hubiera sido pedirle eso oiga partida a partida indique usted de acuerdo a la prórroga presupuestaria

si hay disminución en el caso de si hay ampliación cómo se va a hacer etcétera esto es lo que

tampoco creo que lo hemos resuelto del todo con la enmienda de totalidad que había y con la enmienda transaccional posterior pero en cualquier caso si estamos de acuerdo con es aunque no lo sea en la enmienda transaccional aunque no lo diga específicamente en la enmienda transaccional lo podemos decir aquí se lo podemos pedir y que traiga a esta cámara que remita lo antes posible cuál va a ser la evolución de las partidas del año dos mil trece de acuerdo al presupuesto prorrogado del dos mil doce

compacta porque si tiene que hacer una adecuación de los gastos a los ingresos tendrá que hacer una previsión de gastos y de ingresos

nosotros hemos suscrito esa enmienda transaccional porque hemos querido ponerle también una limitación

determinadas áreas que son muy sensibles para nuestra política

en el año dos mil doce y ahí hemos señalado algo que ustedes también han compartido en relación a los servicios públicos a las políticas sociales a la promoción económica y al empleo

en la línea de lo que también hemos acordado hemos suscrito con el partido nacionalista vasco ese acuerdo para el año dos mil catorce queremos que en el año dos mil trece el comportamiento presupuestario

sabemos que hay menos ingresos que en el año dos mil doce que hay que hacer una adecuación pero que no afecte a esas materias sensibles que son fundamentales para le bienestar de la ciudadanía o para el empleo y para la promoción económica

si se hubieran hecho los deberes antes tampoco tendríamos por qué estar en esta situación hubo la oportunidad en dos ocasiones de hacer una reforma fiscal que hubiera

más recursos a este gobierno para poder haber atendido mejor las necesidades presupuestarias

saliera adelante hubo una mayoría en esta cámara que la rechazó

que está de acuerdo pero obviamente el dos mil trece será un año perdido

una política presupuestaria diferente a la que se proponía en los presupuestos que se retiraron para este año y en la que también

de los que realmente se necesitaban bueno nosotros estamos en la línea de lo que se ha planteado en esa enmienda transaccional y lo único bueno pues que se aclare o que se pida desde luego nosotros lo pedimos nos unimos

también estamos de acuerdo a que se nos dé una información detallada de cuáles son las previsiones de gasto que tiene el gobierno
sobre las partidas del presupuesto prorrogado muchas gracias prieto jauna eskerrik asko

esan zion usted va a ver a lo largo del año que vamos a adaptarnos al objetivo de déficit beraz

ekar litzakeen arazoak saihestuz la actual prórroga presupuestaria se está ejecutando con la prudencia que aconseja

de que las cuentas públicas desequilibradas acaban afectando negativamente a la actividad económica del país el cumplimiento y el rigor

financiera es lo que está inspirando la gestión de este gobierno vasco no lo duden ninguno de ustedes no lo dude señor damborenea

durante el presente ejercicio dos mil tres se está ajustando tanto a los ingresos estimados para el ejercicio dos mil trece como a nuestra capacidad de endeudamiento

de déficit y deuda pública acordados con el estado español alderdi popularra ekimena aurkeztu duen alderdia alderdi sozialista

hitza maneiro jauna sí gracias presidenta únicamente para decir que votaremos a favor de la transaccional que han firmado los diferentes grupos

yo en cualquier caso le agradezco al señor prieto el apoyo a la transacción y en el fondo a la iniciativa que nosotros hemos presentado

lo habría entendido cuando yo digo que estamos ejecutando un presupuesto al que le faltan mínimo de ingreso ochocientos millónes yo en aquella interpelación le recordaba al señor consejero por ejemplo que según este presupuesto que está ejecutando

es de doscientos millónes de euros y sin embargo todos sabemos que el pago de la deuda de este año es de más de cuatrocientos millónes de euros

en este parlamento durante todos estos meses que se va a acabar el año sabemos exactamente de dónde se está sacando el dinero o dónde se está recortando qué partidas se recortan para financiar otras que se están incrementando y se van a incrementar por eso hablábamos de transparencia

es que la ejecución presupuestaria es cuenta a cuenta no hace falta repetirlo en la transacción que hemos firmado pero es evidente que la ejecución cogemos la

y viene cuenta a cuenta y por eso he podido poner hoy el ejemplo del pago a la seguridad social de tres veces la cantidad presupuestada pago digo claro sin modificar nada el presupuesto aquí para eso no hace falta traer aquí una ley

y hacer las modificaciones y plantear las modificaciones adecuar la prórroga presupuestaria

y yo a bildu le tengo que decir una cosa solo por recordarla los principios de estabilidad presupuestaria de legalidad presupuestaria

vienen de antes son obligaciones legales de antes son obligaciones en fin si se quiere estar en el euro

viene de aquellas fechas de cumplir esos requisitos

pues la estabilidad presupuestaria por lo tanto esa obligación esté en la constitución o no esté en la constitución es su obligación

cuando el partido nacionalista vasco nos dice que se cumple los presupuestos del país vasco

es obligatorio ejecutar los presupuestos de acuerdo a la legislación de estabilidad presupuestaria

que esto de que cumplimos nuestra ley es harto dudoso porque

en el ingreso que todos sabemos que no es y en el gasto que no sabemos cuál va a ser pero sabemos que no cuadra

y de derecho porque la legislación de estabilidad presupuestaria obliga a ejecutar y evidentemente a consignar

cosa que hasta la fecha el gobierno vasco en esta ejecución presupuestaria que nos está remitiendo a este parlamento

por eso digo que me le alegro mucho de que el grupo nacionalista vasco

le diga al gobierno incluso al señor consejero cuando nos dijo que no pensaba hacer nada ni adoptar ninguna directriz en este sentido

y que si el gobierno vasco se va a gastar dineros sin tener consignación presupuestaria

y que no se puede hacer y que eso atenta contra

pero también de nuestra propia legislación presupuestaria y lo que nosotros queremos saber que es la primera obligación de los parlamentarios de control a un gobierno es saber en qué se está gastando el dinero

y nosotros hoy con la ejecución presupuestaria que nos remite el gobierno vasco no sabemos en qué se está gastando el dinero y en qué no se está gastando tampoco porque a lo más que podemos acceder es saber que no se ha ejecutado

con lo cual no sabemos exactamente por ejemplo de qué partidas se va a recortar dinero para pagar los más de doscientos millónes de deuda que no tengo duda de que este gobierno lo va a pagar contra qué partidas

porque es que como seguimos con el mismo presupuesto global es imposible saberlo y eso es lo que nosotros estamos planteando hoy aquí

tenemos derecho y obligación de saber

qué es lo que no se va a ejecutar y yo pues bueno pues agradecerles a todos que todos parece que estamos de acuerdo en esto
y esperar que el gobierno lo cumpla cuanto antes nadas más y muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna

señora presidenta señor damborenea lo más transparente y lo más práctico es que este gobierno una vez que retira el proyecto de presupuestos y tiene que funcionar con la prorroga presupuestaria

en función de los ingresos que preveía y dando a conocer cuál iba a ser la evolución de gasto

bajo los instrumentos que tiene y eso sería lo razonable pedirle eso todo lo demás es un poco pedir cosas como muy genéricas porque efectivamente

cuál es la evolución no se sabe qué control

tiene este parlamento por lo tanto esto es lo que yo le decía antes que no interpretaba o no entendía que estuviera reflejado ya no solo en su iniciativa tampoco en la enmienda

yo creo que esta es una petición que perfectamente se le puede hacer en este momento a este gobierno y es que nos dé una evolución de las partidas

para saber efectivamente dónde quiere mantener el gasto dónde quiere recortar porque si quiere hacer otro tipo de gasto eso ya tiene otro camino en segundo lugar me parece muy bien que en la enmienda transaccional se haya reflejado

políticas que suscribimos esta enmienda transaccional las políticas de servicios públicos políticas sociales de promoción económica y de empleo hay que protegerlas

a lo que significa el presupuesto del dos mil doce y la prorroga

ese es el sentido que le hemos dado cuando se ha hecho esa enmienda transaccional y si esto lo compartimos

lo compartimos en la práctica me parece que en la teoría sí y en tercer lugar

obligación legal de estabilidad presupuestaria pero

en boca del partido popular es una invocación un poco innecesaria porque fíjese que ha ocurrido dos cosas en el año dos mil doce que también existían

han sido fundamentalmente donde gobiernan ustedes donde se han saltado

límites de la estabilidad y luego además se han autopremiado con una relajación del déficit mayor allí donde más han incumplido que donde se ha hecho el esfuerzo por ajustarse a las posibilidades económicas por lo tanto la verdad es que suena un poco fuerte lo

y que hoy aquí se nos está hablando de que desde el partido socialista que igual el tema era pedir explicaciones que el gobierno explicará la ejecución presupuestaria y cómo habían hecho loas modificaciones si no he entendido mal

nosotros en nuestra enmienda pedíamos que el gobierno explicará qué criterios había seguido

y ahí podríamos ver si tenían o no tenían razón de ser

alguno incluso no ha leído nuestra enmienda respecto a la enmienda que finalmente

y upyd que también ha indicado su voto a favor hablamos de los servicios básicos y yo sí quiero hacer una pequeña observación

hablaba de cumplir los objetivos y la financiación global del año dos mil doce es decir poniendo en valor aquel presupuesto que su gobierno había presentado y aprobado y pasamos de cumplir los objetivos y la financiación a cumplir los objetivos de financiación que que yo sepa

no es lo mismo no es lo mismo señor prieto tenga cuidado porque sus objetivos no sé si van a seguir los objetivos que usted dice defender no sé si van a estar

en este nuevo presupuesto que al parecer tenemos en vigor

gogora arazi behar dizuegu la estabilidad presupuestaria viene antes de la ley

la ley de estabilidad presupuestaria y algunas de las condiciones que nos pone sino hable usted con unos cuantos y yo diría que bastantes

financieros se ven y se las desean para cumplir algunas de las cuestiones de la ley de estabilidad presupuestaria porque están preparados para otro tipo de instituciones

damborenea jauna zuk esandakoari en cuanto al pago de la deuda decía que no tiene ninguna deuda de que la va a pagar y ahí

duda porque tendrá usted continuamente presente el artículo ciento treinta y cinco la modificación que se hizo de la constitución efectivamente que antes se decía

de la deuda fuera prioritario en relación con todos los demás

los que se determinaron en el consejo vasco de finanzas celebrado en octubre de dos mil doce más el endeudamiento autorizado

del uno coma dos por ciento sobre el producto interior bruto de euskadi y un objetivo de deuda de un doce coma dos por ciento sobre el producto interior bruto también de euskadi en cuanto a los gastos

el consejero y se lo he comentado también antes el proyecto de presupuestos generales del dos mil trece es el marco de referencia en cuanto a gastos y en cuanto a la información y a la transparencia efectivamente a esta cámara mensualmente y trimestralmente información de todas las modificaciones presupuestarias realizadas y ejecución

y trimestralmente información sobre la situación presupuestaria

hace muy bien sus deberes desde que cogió el gobierno vasco eskerrik asko